sí en primer lugar satisfacción por haber llegado a esta enmienda de transacción entre el grupo socialista grupo nacionalistas vascos y grupo popular

claro de qué hablamos estamos hablando de productos artesanales y lo artesano no

va en la forma de producir de elaborar y de transformar el artesano

industrial pero no tiene nada que ver el volumen por lo tanto

probablemente no podemos hablar de algo superior a eso porque si el concepto lo tenemos erróneo a dónde vamos decir que seguimos apostando y apostamos por la defensa de los productos artesanales de nuestra comunidad autónoma que creemos que aportan

creo que como se ha dicho aquí casi todas las regiones y comarcas tienen sus productos artesanales que vienen de muchísimos años de

esa cultura de unos a otros y es un valor que no lo podemos perder tenemos un problema porque efectivamente bruselas no tiene una regulación específica para estos temas

estados miembros o regiones se le han solicitado por lo tanto por eso creemos que el gobierno en este caso tiene un campo para trabajar y poder

más concreta y específica en nuestro territorio por lo tanto creemos que la enmienda que hemos firmado es muy posibilista

a veces no sabemos si habla del sector primario de esta comunidad autónoma o nos habla de otro mundo que

presidenta los socialistas vascos estamos satisfechos con haber podido llegar a una enmienda de acuerdo con el pnv

posible fórmula para que sin contravenir las normas y la legislación europea pudiéramos poner en valor la producción artesanal vasca esa es la realidad

entendíamos nosotros más allá de filosofías con las que podremos compartir argumentos algunos de los planteamientos o muchos de los planteamientos que ha hecho el señor lazarobaster pero que realmente

ningún vértigo para hablar sobre las cosas que usted

ninguno los socialistas le hemos dado la explicación de por qué no estábamos de acuerdo con su moción lo que sí le pedimos es que no intente en esta cámara plantearnos siempre experimentos

y ajenos a lo que es el mundo en el que vivimos que es el mundo en este caso en europa y con una legislación europea que está por encima de la normativa vasca mire no puede plantear que seamos firmes y que haya firmeza en

planteados cuando está poniendo esos planteamientos firmes frente a la absoluta inseguridad jurídica

a nuestro modo de ver y la producción artesanal alimentaria representa buena parte de los recursos económicos de las familias del medio rural

que su regulación y la dotación de un distintivo no solo reconoce y fomenta un sector que se encuentra estrechamente ligado a la conservación de la cultura alimentaria del país vasco y a la preservación de recursos naturales sino que además procura a los productos alimentarios

un valor añadido que eso es lo importante el valor añadido que tienen los productos artesanales mediante unos modelos de gestión y de producción más respetuosos con el medio ambiente que otros por lo tanto para nosotros la compatibilidad entre la normativa vasca la normativa legal que tenemos en el país vasco con la legislación europea es el quid de la cuestión lo que tenemos que intentar salvar en el día de hoy

que la comunidad europea le planteó cuatro modificaciones de cuatro artículos y no fueron suficientes

luego estaba el artículo treinta y cuatro que es el que ha llevado al nuevo decreto

decreto del ciento veintiséis por lo tanto no hagamos quimeras que no llevan a ninguna parte excepto a plantear falsas expectativas para que luego los productores artesanales vascos

la legislación europea no le permite a usted hacer estos productos

a usted a nosotros por haber pactado una enmienda que no da seguridad jurídica

y comprendiendo que su moción puede llevarle a extremos y a esas quimeras que ha veces nos plantea aquí y que yo lamento porque usted se ha enfrentado a lo que es una enmienda transaccional muy posibilista

promoviendo un engaño comercial en absoluto qué engaño comercial pero de qué va esto

sus límites esos no producía ningún engaño comercial por qué

y que nos achacaba a nosotros en fin yo creo que hay que ser más realistas de verdad que con la enmienda que hemos presentado y que vamos a apoyar

intentamos evitar esa entelequia en la que usted nos pretendía meter

europeo al que pertenecemos una normativa europea una normativa superior y por lo tanto hay que ser obedientes obligados a un principio jurídico de actuación y debemos de compatibilizar esa normativa eso es lo que nos traía en el día de hoy y por eso esta instancia

la posibilidad de esa compatibilidad de las normativas técnicas y no espere a que le venga de europa

atienda a lo que es el hoy y son las normativas técnicas para esa producción artesanal y hacerla viable que es de lo que se trata gracias eskerrik asko

mire su modelo agrario y el nuestro

no lo compartimos yo tampoco comparto lo de de que los agricultores y los artesanos son pequeños burgueses

capitalistas trabajadores de todo pero no compartimos y en cualquier caso usted sabe

lo más importante de lo que hemos transaccionado usted está de acuerdo en apelar a las instituciones europeas a que lo reglamenten

usted lo sabe porque por otro lado usted no niega el decreto lo acepta el decreto tal como viene lo único que pone es cuotas

mi pregunta es si aceptamosun tres por ciento del cupo que por cierto la unión europea no lo aceptaría para nada solo faltaba que encima

ese tres por ciento que entra ese puerro de letonia artesanal o ese queso frisio artesanal

estaríamos engañándoles solo un tres por ciento pero estaríamos engañándoles es decir no está proponiéndome una solución ni en el debate usted está acusándonos de algo que no es cierto parece que ha hecho el decreto para querer engañar

a la agricultura familiar de pequeño formato eso es lo que dice no dice el tres por ciento de dos hectáreas o de quince puerros de cuota

si somos europeos en cualquier caso lo somos con las consecuencias a veces que nos disgustan como esta por eso tampoco podemos poner cuotas insisto que va todo junto en el paquete y no me confunda máximos y mínimos con los máximos y mínimos de subvenciones por ahí no usted sabe que los máximos y mínimos de subvenciones son por un lado para definir el concepto de agricultor

y por otro unos máximos precisamente para poder repartir más justamente las subvenciones que percibe la agricultura porque si no sería enormemente injusto el sistema de reparto de subvenciones eso no son cuotas eso son repartos de subvención justa cuota hay en la leche y cuota hay en la leche porque

el consumo y la producción se intentan ajustar para que el productor pueda tener rentas el beneficiado de la cuota láctea es el agricultor

todavía no hay excedentes todavía no hay excedentes en producción artesanal de hecho todavía no hay producción artesanal cualificada y la clave de toda esta historia la clave de este decreto más o menor digamos

está en las normas técnicas de cada producto las normas técnicas de cada producto serán las que marquen capacidades de producción modelos de producción y además la van a hacer los productores que se quieren apegar a este modelo y lo van a hacer en el consejo

no esté mirando este decreto como un gran engaño a los consumidores que no es así por cierto si iparralde y nafarroa se vienen y se adhieren a este decreto

o están fuera del tres por ciento de esto no hemos hablado podíamos puede ser otro tema para hablar después porque

en cualquier caso como conclusión están permanentemente con el nuevo modelo económico el nuevo modelo económico el nuevo

un gasto para definir el nuevo modelo económico y el único que realmente van concretando poco a poco de todo el sistema económico es el sistema del sector primario y de momento todo lo que estamos viendo su sistema económico nuevo del sector primario es repartir la cuota entre los productores para que el sistema de esa manera se equilibre a ver si ese es el nuevo modelo económico para todas la sociedad vasca muchas gracias

señorías señoras consejeras buenos días egun on

que se ha presentado definitivamente en una enmienda de transacción que mi grupo ha querido traer para su debate definitivo en esta cámara

con el fin de superar los problemas de inseguridad detectados en la zona rural alavesa

por cada vez más personas por cada vez más instituciones por cada vez más colectivos de muchas categorías profesionales vecinales institucionales

en la interpelación que este parlamentario presentaba a la señora consejera de seguridad en el pasado pleno de control

cuestión planteada o con las denuncias planteadas por varias vías por un lado alcaldes y

fundamentalmente de la rioja alavesa pero también de otras zonas como añana ponían a través de un escrito enviado al departamento lo siguiente

el último año tanto en viviendas como en explotaciones agrarias

sin protección al estar centrada la presencia policial en tres puntos las comisarías de

en que las patrullas que tengan que acudir a un incidente tienen que desplazarse desde la comisaría de llodio también decían que en el caso de la montaña alavesa y añana las patrullas deben acudir desde vitoria

infradotada como también reconocían y decían que han denunciado los sindicatos de policía autónoma en repetidas ocasiones exigían a la consejera de seguridad que cambie su planteamiento con respecto a álava y se esfuerce en realizar una labor preventiva reclamaban una mayor presencia

y los delincuentes no tengan el campo libre en las zonas rurales de álava

y se han llevado todo decían exigían a la consejera de seguridad

de terreno con puntos más vulnerables alejadas de las principales vías de comunicación y con segundas residencias o edificios desocupados partes del año y también ellos hablaban de la creación de patrullas rurales para realizar una labor disuasoria que evite y garantice la máxima seguridad en todas las zonas rurales del territorio alavés bien esa es una posición una denuncia

que recogen los alcaldes de la población de los vecinos

el sindicato decían y denunciaban también estas circunstancias

más comisarías o que se reabran las que ya existen secundan muchos de ellos

de muchos partidos la idea del sindicato del policía erne para mejorar respuesta de la ertzaintza a los delitos

hemos leído en medios de comunicación alcaldes del psoe y también del pnv que comparten la necesidad de reforzar

expresiones estamos un poco abandonados no se ven patrullas se dice el alcalde de ribera baja dice que hace tiempo pide al gobierno vasco

hay planteamientos de estas características cada día más en relación con la seguridad en las zonas rurales de álava cada día más cada día por más representantes y por más responsables institucionales de estos sitios

federación de vecinos de álava se ha sumado a las peticiones dirigidas al departamento de seguridad para que abra más comisarías en álava poniendo el acento en el refuerzo de salvatierra y en la apertura de una nueva comisaría

y ha sido erne el sindicato vasco de policía

desde hace ya tiempo ha mostrado su posición desde la profesionalidad y del conocimiento de esta situación generada quien ha solicitado que se incrementen que se refuercen

y que se estudie abrir más comisarías o reabrir

esto lo dice la propia ertzaintza a través de uno de sus sindicatos que trabaja a

en relación con la situación existente decía un representante de este sindicato a propósito de la falta de dotaciones y de seguridad en la zona decía lo cierto es que rioja alavesa tiene

salen a la calle el día que más tres patrullas pidiendo refuerzos del resto del país vasco cuando lo ideal es que hubiera dotación para cinco patrullas o seis en todos los turnos

cubren una o dos patrullas es decir es una situación que plantean los propios profesionales en la concentración que erne realizó en septiembre pues

de laguardia por la falta de plantilla y la falta de seguridad que en este caso presenta la comisaría de laguardia y que venimos denunciando decían va desapareciendo plantilla

ha habido tres movimientos de plantilla y en ninguno de ellos se ha mandado personal este año no lo dice el partido popular señora consejera señores del grupo nacionalista vasco eso lo dice la policía autónoma vasca los sindicatos de policía tratando entiendo yo de describir una realidad que ellos contemplan bueno los datos

el territorio histórico más extenso de euskadi y solo tiene tres comisarías siendo el más extenso con mucho de euskadi tres comisarías vitoria laguardia y llodio

once comisarías cada uno de los territorios históricos once es decir en álava el número de ertzainas por kilómetro cuadrado es de cero coma dos

en bizkaia es de uno coma nueve y en gipuzkoa de cero coma nueve es decir en álava hay

mientras hay uno prácticamente en gipuzkoa y en bizkaia es

que es un desequilibrio sabemos que hay que conjugar factores es el factor extensión hay que conjugarlo con el factor población eso es así pero el desequilibrio es muy importante

en el mapa de comisarías de euskadi ya se ve bien las de álava con toda la extensión que tiene y como está bizkaia y gipuzkoa en relación con la extensión bueno al final

de contribuir después de esa interpelación y de la descripción de esa situación y de hacernos en este parlamento pues también transmisores de esa sensación y de esas inquietudes

una moción después de la interpelación que sustanciamos el pasado pleno de control a esta cámara y hemos presentado una moción y hemos llegado a un acuerdo con el grupo socialista

con las cuestiones que abordábamos en la enmienda de transacción

décimos que el parlamento vasco insta al departamento de seguridad del gobierno vasco a reforzar la seguridad en las zonas rurales de álava con la dotación de seis patrullas permanentes en la comisaría de laguardia no nos lo inventamos nosotros eso nos lo han sugerido nos lo han

propia policía autónoma en relación con la necesidad de que esas sean

las patrullas que puedan ser permanentes el parlamento vasco insta al departamento de seguridad del gobierno vasco

de ubicar nuevas comisarías en la zona rural alavesa y o a reabrir la actualmente cerrada de

estamos hablando de un texto de estudio instando al gobierno a que esos planteamientos que vienen también

o de representantes de asociaciones de vecinos se estudien se analicen y se vea la posibilidad de que eso se lleve a cabo después de peticiones expresas además de alcaldes en relación con esta cuestión también pretendemos que el parlamento vasco inste

a que realice y envíe al parlamento durante el actual periodo de sesiones un plan de prevención de robos en zonas agrícolas

entendemos que debiera ser asumida con normalidad y con tranquilidad por el departamento en relación

de hacer un trabajo racional de no ser maximalistas además de identificar estas peticiones con las peticiones que hemos visto

hemos leído que se realizan y hemos oído y hemos escuchado y nos han explicado

es posible que no salga aprobada esta enmienda de transacción en cualquier caso estamos hablando de lo que ocurre señora beltrán de heredia de lo que ocurre en álava y el problema
si se no se toman medidas seguirá existiendo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

según la memoria del ministerio fiscal español en referencia a las causas incoadas por delitos de robo en casa habitada y local abierto al público en el estado español

del veinticuatro por ciento en araba algo menos del diecisiete coma uno con respecto a esos otros delitos que creo que preocupan más que son los

el incremento de las incoaciones de la fiscalía en todo el estado fue del ocho por ciento mientras que en araba hubo un decremento un descenso del cuatro coma tres para seguir con esta comparativa los vizcaínos y vizcaínas tendrían que estar bastante más preocupados ya

se produjo una subida del veintiuno por ciento suponiendo además una gran cantidad de hechos que lo que hacen es arrastrar la estadística de toda la comunidad autónoma la consejera dio otros datos esta vez en base a

fue más segura que el dos mil doce con un seis coma ocho de delitos menos y concretamente en robos con violencia dijo además que se habían descendido

campanas al vuelo pero que yo considero que hay que tomar en consideración

dijo además que en el caso de laguardia para una población de trece mil quinientos habitantes aproximadamente hay noventa y cinco ertzainas

incluso en relación de ertzainas por kilómetro cuadrado a pesar de la

por delante de otras comisarías como puede ser la de laudio usted incorpora otros datos bueno tendrá que discutir en todo caso con la consejera pero

ni en extensión pero sin embargo hay cuatro patrullas

para aiaraldea ahora se solicitan seis en la transaccional ni

ari delako eta hori arduragabekeri galanta iruditzen zait en la interpelación que mantuvo con la consejera señor barrio decía que los datos

si los datos se pueden manipular imagínese usted las sensaciones las percepciones percepciones de seguridad que usted invoca de algunos sectores o de algunos responsables institucionales para no hablar de seguridad real usted

en una seguridad percibida o una inseguridad percibida y es que cuando se habla de sensaciones de percepciones

lectura subjetiva pensaba que usted habría traído algún dato objetivo

los datos tal vez contradicen su propuesta hace aproximadamente un año el señor maroto trajo una iniciativa similar a la que

nuevamente hablaba de percepciones la ciudadanía está preocupada alarmada atemorizada

y con su propuesta parece que dan respuesta a esa sensación ofreciendo

más presencia pero si la sensación se traslada a todo el territorio entonces qué sucede más policía para todo el territorio un cincuenta por ciento más de patrullas para todo el territorio cuántas comisarías hacen falta

o punitivo y hoy tengo que mantenerlo

exacerbar la presunta inseguridad en esa zona como arma creo

estados de alarma que realmente no se sostienen con esas tasas y con esos ratios

y esta actitud nos parece realmente irresponsable si no le gusta hablar de datos bien hablemos de política

el fiscal superior del país vasco el señor juan ramón calparsoro nos dijo en una comparecencia en esta misma casa que la criminalidad

pueden encontrarse en factores múltiples no siendo descartable uno de ellos la crisis económica y si tenemos que encontrar responsables en la crisis económica bien enfrentemos esa situación

desarraigo exclusión social que ciertamente puede estar en la base del delito sin duda hay que mejorar hay que anteponerse hay que prevenir y en su momento actuar con determinación

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi el concepto de seguridad que propugnamos los socialistas se basa

prevención que consideramos tiene que tener su origen en el terreno de la educación en la intervención social en la prevención de la exclusión social pero somos conscientes que estas medidas por sí solas no solucionan el problema de la delincuencia por eso consideramos que los cuerpos policiales también

para impedir la comisión de delitos contra bienes y personas este es el modelo que reservamos para la policía vasca el modelo que este gobierno

con los ciudadanos y ciudadanas para implementar este modelo

real efectiva de la policía en los espacios públicos esta será la garantía de la labor preventiva

esa labor de prevención se complica en un territorio como el alavés

y concentrado en la capital una zona rural con población dispersa en pequeños núcleos

esta realidad hace que sobre todo en la amplia zona rural

para lograr que la comisión de delitos no se multiplique a condiciones específicas medidas ad hoc no sirve en este caso el café con leche para todos en los últimos meses las quejas de la población transmitidas a través de alcaldes concejales y diferentes agentes sociales han arreciado estas quejas

pero han sido más intensas en ella delitos concretos contra bienes y personas han desencadenado la preocupación social se ha creado una preocupación social que no queremos magnificar pero que creemos tiene una base real que no está provocada por el sensacionalismo sino por una percepción ciudadana cierta

reales ante esta realidad no debemos ni podemos mirar hacia otro lado no nos engañemos cuando alcaldes concejales agentessociales

es tomar nota y dar las respuestas adecuadas respuestas que recuperen la confianza de los ciudadanos de forma que las personas se sientan protegidas por la administración

que comprendemos la complejidad de la labor preventiva en la extensa y poco habitada zona rural alavesa pensamos que esa complejidad se supera con más eficiencia

entre otras cosas el pasado veintiuno de febrero la consejera en respuesta a una interpelación en un pleno de control nos decía que en estos momentos en la comisaría de laguardia

toda la comarca de rioja alavesa y gran parte de la montaña nosotros pensamos

pero no nos puede asegurar la consejera creo yo que esa dotación se mantenga por ejemplo en el mes de julio cuando hay un número importante

que están disfrutando de sus vacaciones lo que ocurre en realidad es que esa dotación se reduce durante esos meses

en los que como decía las vacaciones de los ertzainas

disfrutando de sus vacaciones porque

que están de vacaciones son sustituidos inmediatamente por los efectivos reales

sigan siendo las cuatro patrullas y estas se suelen reducir a tres o incluso a dos nos hemos centrado hasta ahora en la zona que abarca la comisaría de laguardia pero la misma preocupación

de la provincia el valle de valdegovía por ejemplo fundamentalmente atendida desde la comisaría de laudio y también podríamos extender esa misma impresión

llanada y resto de la montaña atendidas desde vitoria es un hecho constatable

la presencia real de la ertzaintza en álava se ha reducido

aquí se cerró la de agurain por otra parte se nos puede achacar que

alavesa rompiendo los ratios que se aplican en otras zonas más urbanas por ejemplo pensamos que en este punto también la especifica situación de la zona rural cuenta es aplicar medidas concretas o situaciones concretas en todos los pueblos a los que me estoy refiriendo no hay policías locales

y de esa manera complementar la labor de unos y otros son elementos diferenciales que van en contra como

en estas zonas rurales son hechos como decía ciertos son hechos reales son hechos constatables desde nuestro punto de vista estos hechos ciertos son los que junto a la comisión de diversos delitos han desencadenado las reacciones a las que me he referido al principio para nosotros la conclusión es sencilla es necesario reforzar de forma real

por eso proponemos medidas concretas que vayan dirigidos a conseguir tres objetivos realizar una prevención más eficiente de los delitos responder más rápida y eficaz cuando esto se produzcan y devolver la confianza y la sensación de cercanía de nuestra policía con la ciudadanía y por eso hemos firmado con el partido popular la enmienda de transacción que ha dado cuenta el señor barrio nosotros aquí lo que queremos cuando hablamos de seis

un ejercicio teórico estamos hablando de cosas concretas la misma consejera en ese pleno de control al que me he referido habló de que hay momentos en los que

que están trabajando en el entorno que le corresponde nosotros lo que queremos con esto es que eso se consolide que esa imagen que se pueda dar

con algo que decía la consejera que ya de manera esporádica se estaba haciendo

se concrete se complemente no queremos hacer un incremento artificial un incremento

que no tenga que ver con datos reales o que no tenga que ver con cuestiones concretas y en las otras dos proposiciones que hacemos

son estudios lo que queremos es que se tome como decía antes en consideración lo que se está

se está percibiendo son hechos que se están percibiendo como reales que son y hay que darle respuesta y no queremos respuestas no queremos respuestas señor arzuaga que magnifiquen la situación y mucho menos

ya están como dijo la señora consejera en algunos momentos actuando el que se hagan estudios para que se vuelvan a implementar medidas que había antes como la comisaría móvil o una nueva comisaría permanente o que se abra a una comisaría que se cerró creo que no son cuestiones que

son medidas que apuntan a lo que yo decía antes son medidas que apuntan

a que los ciudadanos las ciudadanas recuperen confianza se sientan seguras

a un acuerdo y lo hemos intentado con el grupo nacionalista el grupo que apoya al gobierno

porque creo que no hay razones que expliquen

que no se adopten estas medidas que como digo unas son de estudios son de profundizar en la realidad para dar respuestas acordes a esa realidad que tengamos y una

podíamos haber sido más flexibles incluso porque creemos que hay que dar medidas concretas no vale exclusivamente con decir que ya las veremos que ya estudiaremos que hay planes no lo que tiene que haber es medidas concretas que se recupere esa confianza medidas concretas que se perciba por parte de los ciudadanos de las ciudadanas

a sus preocupaciones y en este caso insisto no queremos ni muchísimo menos

preocupación ciudadana cierta y además cierta y basada en hechos reales y en hechos concretos y eso es lo que queremos con nuestra moción
tratar de solucionar muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

aportadas por la consejera de seguridad en el debate de la interpelación que ha originado la moción que hoy discutimos

veo que no es así que incluso redobla sus esfuerzos trasladando a las juntas generales de álava este mismo tema y puesto que usted y veo que también ahora el señor unzalu viene sosteniendo

como el pasado día veintiuno en el pleno de control como en el despliegue mediático que han realizado en relación con este asunto como viene haciendo determinadas afirmaciones respeto de una pretendida insuficiencia en la atención

a la cuadrilla de rioja alavesa me gustaría que pudiéramos aclarar definitivamente esas criticas uno habla usted

oleada de robos señor barrio el término oleada tiene multitud de acepciones significa ola grande embate y golpe de ola

muchedumbre tropel e incluso dicese de la persona

no sé cuál es a la que usted se refiere pero mire tengo que decirle que en rioja alavesa

ni siquiera en sus fiestas patronales se concitan muchedumbres ni tropeles ni la cosecha de aceite aun siendo excelente es todavía muy abundante

de esos robos a los que usted se refiere creo que haya llegado la sangre al río como para tener que ungir a nadie ahora en serio señor barrio

a usted le parece que once coma sesenta y siete robos en rioja alavesa por cada mil habitantes y año

más bajas de la comunidad autónoma da para hablar de oleada de robos a usted le parece que cinco coma tres

en rioja alavesa el más bajo de toda la comunidad autónoma de euskadi da para hablar de oleada de robos a usted le parece que habiendo bajado

alavesa precisamente en el año dos mil trece un tres coma veinticinco por ciento respecto del año anterior da para hablar de oleada de robos seamos serios señor barrio dos habla usted de preocupación de los alcaldes hombre será a lo sumo de los cinco alcaldes del partido popular de los quince que tiene rioja alavesa dice que los cinco que la bastida que baños que yécora que navaridas y oyón le han trasmitido

no cinco nueve elciego elvillar tripal lanciego lapuebla leza

y lo que me trasladan es normalidad señor barrio qué quiere que entremos en una disputa de número de alcaldes y de siglas tres

de inquietud en la población como si esa pretendida desazón alcanzara a la totalidad de las gentes de rioja alavesa mire aún concediéndole que todos los habitantes de esos cinco municipios

desazonados por la situación que no es así pero en todo caso sería el cuarenta y uno por ciento de la población de rioja alavesa

que no manifiesta ninguna inquietud cuatro habla usted de la deficiente

que deja zonas del territorio alavés desprotegidas le tengo que negar la mayor porque digo yo que tan deficiente

como cuando ya le explicó la propia consejera

algún otro portavoz que me ha precedido el índice de delitos descendió en un seis coma ocho

y en cuanto a dotaciones que parece ser otro de los aspectos que le inquieta señor barrio sepa que precisamente nuestro territorio el alavés

sino por encima también del resto de territorios mire comunidad autónoma vasca un ertzaina por cada cuatrocientos cuarenta habitantes gipuzkoa un ertzaina por cada trescientos noventa y ocho habitantes

un ertzaina por cada cuatrocientos setenta y uno habitantes araba un por cada trescientos noventa y siete y en rioja alavesa un ertzaina por cada ciento treinta y seis habitantes nos dice además que en la actualidad

en esas zonas rurales de araba es inferior a la de bizkaia y a la de gipuzkoa

nuestro territorio el más extenso pues es que señor barrio nuestro territorio es el más extenso pero es que también es el menos poblado entonces qué pretende usted

explíquemelo cinco habla usted de la denuncia del sindicado erne en este mismo sentido

y es si está usted actuando como portavoz sindical de erne o no porque el día pasado en el pleno del control no no aclárelo nos decía en esta misma tribuna

que vive rioja alavesa decía literalmente la hacen ellos refiriéndose al sindicato y no yo usted pero a renglón seguido nos anunciaba que acababa de hablar con ellos y que nos transmitía su queja

yo espero que esa moción que ustedes presentan obedezca únicamente

habida cuenta de que las reivindicaciones sindicales señor barrio ya tiene su propio cauce dentro del departamento de seguridad y sexto y último habla usted de la necesidad de reforzar la labor preventiva y disuasoria de la ertzaina

lo que está llevando a cabo la consejera de seguridad a raíz del cambio de estructura y de organización en la policía vasca

que usted conoce perfectamente puesto que la consejera lo viene explicando en sede parlamentaria con profusión luego señor barrio si queda acreditado que no hay oleadas que los delitos de robo en rioja alavesa no son más que en otras zonas del país que no hay una inquietud generalizada en la población de rioja alavesa que no hay preocupación en todos los alcaldes de la cuadrilla salvo en los cinco de su cuerda

sino que las estadísticas avalan todo lo contrario que no hay supongo suplantación por su parte de ninguna portavocía sindical

como reflejan los datos expuestos y como sostiene por cierto su propio alcalde de oyón uno de los firmantes de esa famosa carta cuando reconoce sic la ertzaina trabaja de forma incesante en la prevención de los delitos entonces señor barrio de qué estamos hablando

esta moción si su argumentación no se sostiene en ninguna de las partes por qué generar señor barrio alarmas injustificadas qué finalidad persigue

no es consciente además de que esta falsa sensación que usted transmite de dejación de abandono de falta de seguridad en rioja alavesa

un cierto efecto llamada para los delincuentes señor barrio araba en general y la rioja alavesa en particular son lugares sustancialmente seguros

suficientemente protegida la comisaría de laguardia no está por debajo de los ratios que se aplican al conjunto de las comisarías de euskadi

sabemos que estamos tratando sobre un tema sensible somos conscientes como no lo vamos a ser de que todo es perceptible pero hagámoslo desde la responsabilidad dejemos que el departamento de seguridad

dos mil dieciséis que antes citaba siga trabajando en la mejora de la seguridad de las zonas rurales para prevenir la delincuencia en sus distintos modos

desde la profundización en la colaboración con las instituciones locales y agentes sociales ese es señorías el sentido de la enmienda que hemos presentado eskerrik asko

esta moción que ha presentado este humilde parlamentario

mucho además por lo que parece porque usted ya traía preparada la parte graciosa de su intervención lo de la oleada respondiéndome a mí que en ningún momento he hablado de oleada

mi intervención y en ningún momento he hablado de oleada

ha sido para hacer una descripción del diccionario de la real academia o de la enciclopedia que usted haya consultado

que yo no he dicho es decir yo no he dicho la palabra oleada

y muy gracioso pero yo lo que creo es que ha tenido una

pero usted mismo en relación con la intervención en relación con esta cuestión que es muy seria como para hacer las gracias que usted ha tratado de hacer en relación con mi intervención y portavoz sindical pues no yo portavoz ciudadano usted se ha convertido en portavoz del gobierno de defender a ultranza al gobierno

con humildad también en portavoz ciudadano si esa portavocía hace que yo responda o que traslade inquietudes

instituciones o que tienen asociaciones de vecinos o que tiene sindicatos pues claro que sí por qué no voy a poder

traer yo esas reflexiones esas preocupaciones esas sensaciones aquí yo creo que en estas cuestiones no hay que enfadarse tanto es decir no hay que enfadarse hay que analizarlas de que dentro de una semana o que dentro de dos semanas en relación con esta cuestión el departamento

y de publicidad de la consejería de seguridad del gobierno vasco sacará

no sé si jugarme un café o una caña pero estoy seguro

de la policía autónoma vasca quiero decir del departamento de seguridad que dirige la señora consejera sacará alguna medida porque es normal porque cada día

la sensación se está aumentando la preocupación se está aumentando lo estamos siguiendo por los medios

que no esté contrastado en este momento a través de los medios de comunicación mire a día de hoy

saliendo para cuatro zonas que cubrir no lo han dicho es decir y esta semana santa no va a ver ni esas tres patrullas prevén que va a ocurrir

esa situación es decir y se necesita como nos han dicho un mínimo de seis patrullas que

y no habría además los tiempos muertos que se están produciendo en este momento en relación con la falta de asistencia de la policía

es decir son cuestiones que están sobre la mesa son cuestiones que están ahí que nosotros tenemos que trasladar la sensación que no solamente han sido portavoces alcaldes representantes institucionales de mi partido que hay de otros partidos que lo hemos visto días a través de los medios de comunicación que usted mismo lo habrá visto y lo habrá leído es decir

tiene notificación de otros representantes institucionales que no son de los de mi partido en relación con esta cuestión

utilizar esa información desde luego pero hay esa preocupación y hay que dar respuesta a esa preocupación y además en nuestra iniciativa

policial en laguardia que es necesaria que además es que se respalda por lo que han dicho los propios profesionales de la policía y en ese sentido traemos esa inquietud objetiva

en lo que hemos manifestado como una inquietud que también hay y que también han hecho referencia otros representantes institucionales en relación con las comisarías con

una nueva apertura en otra zona de álava desprovista en este momento de comisaría pues bueno

ha matado un poco moscas a cañonazos en relación con su intervención en esta cuestión nosotros

estudiarla ponerla encima de la mesa de la señora consejera y le juego a usted un café que en las próximas semanas alguna actuación en relación con lo que esta moción no va a decir

bai eskerrik asko bueno parece que se recula en algunos de los ámbitos ya que

nadie para justificar esta iniciativa se refiere a datos cierto es que en araba hay más territorio

y entonces me pregunto yo en base a qué criterios a qué elementos a qué parámetros se debe de distribuir unos recursos humanos unos recursos técnicos cuantiosos importantes pero siempre finitos si no se hace en base

qué queda intereses partidarios

me temo que hay bastante de esto detrás de la iniciativa porque

como buenos representantes ciudadanos se habla se dice que en la ciudadanía hay una percepción cierta ha dicho el señor

percepción cierta es un oximorón es imposible que haya una percepción cierta

la percepción será subjetiva la percepción no es real es una percepción sobre algo

tal vez una percepción se corrige haciendo pedagogía el señor barrio dice que habrá que poner en marcha el departamento de marketing y publicidad de la consejería de seguridad bueno me pregunto esta iniciativa

poner en marcha el departamento de marketing y publicidad para aliviar esa percepción

ahorrado el viaje se habla de percepción de los ciudadanos como digo algo incuantificable incuatificable y por tanto peligroso se habla de percepción

viene conectado con la realidad entonces se convierte en una percepción irresponsable pero se habla de datos o de opiniones de fuentes sindicales lo cual ya me resulta absolutamente incalificable nosotros no tenemos conexión con estas gargantas profundas

realmente los intereses corporativos que defienden ya que cada vez me parecen más interesados

y por lo tanto más irresponsables nosotros sí que nos hemos puesto en contacto con alguien que podría hablarnos de la cosa y algunos responsables sindicales

que se saca alguna maquinaria a estos terrenos de labranza y es ahí donde se producen algunos robos identifíquense y póngase una solución pero no sé haga una lectura absolutamente expansiva

de una circunstancia y de una situación que creo que no sucede esaten nuen lehenago momentu horretan eta identifikatzen denean arazoa orduan aktibatu behar da

quienes pretendemos incorporar al debate mesura equilibrio y creo que argumentos basados

en cosas ciertas pues salimos un poco de él porque la tensión se produce entre las partes más radicales pero no obstante yo voy a ir en la línea que he ido en mi primera intervención de tratar de equilibrar de tratar

de medir lo que estamos diciendo porque aquí parece que por algunas intervenciones como que hubiéramos solicitado con la

que estemos diciendo no duplicar triplicar no sé multiplicar por cuanto la presencia policial en

medidas muy concretas seis patrullas que

en muchas ocasiones actúan en esa comarca

que atiende la comisaría de laguardia de eso estamos hablando

o sea no se enzarcen con los discursos para no entrar en lo concreto por qué no discutimos de lo concreto es imposible seis señor agirre es imposible cinco como le hemos propuesto el señor

es desmedido incrementar un veinte por ciento la presencia pues yo pienso que no que no es desmedido pienso que se ajusta a argumentos que es equilibrado que es equilibrado y yo creo que eso es lo importante que tenemos que ver aquí

en mi primera intervención las condiciones de la zona rural alavesa este valle de ayala con unas características demográficas y territoriales concretas

son muy específicas por lo tanto no se pueden aplicar ratios

zonas del conjunto de la comunidad autónoma primera cuestión específica que hay que atenderla territorio extenso poco poblado pero extenso no vamos por supuesto a tener que poner

pero sí esta configuración territorial nos da algunas claves por ejemplo los tiempos de respuesta

no son los mismos por ejemplo los tiempos que se tardan en los cambios de turno si una patrulla está en zambrana en el

va a tener más o menos veinte minutos y otros veinte minutos o veinticinco minutos que cueste

la patrulla que entre de servicio volver a zambrana estamos hablando de cincuenta casi de una hora que

una presencia activa no hay una presencia real esta es una primera cuestión luego las concentraciones urbanas en pequeños núcleos esto también da unas condiciones específicas de atención

en esas zonas en esos núcleos urbanos pequeños y aislados que en un barrio de vitoria por ejemplo y eso también hay que atenderlo y por eso nosotros queremos

en zonas urbanas como puede ser vitoria la margen izquierda o

con las policías locales porque se coordinan porque la prevención también la puede hacer la policía local es decir

para determinar o demostrar la especificidad que tiene

insisto y no estamos pidiendo aquí multiplicar por cinco la presencia no estamos pidiendo medidas muy razonables muy equilibradas

dado en otros momentos que se están dando y nosotros queremos consolidarlo por qué porque es cierto que

hay una preocupación y eso es evidente y no solamente por los alcaldes que se han referido aquí

y por supuesto también representantes institucionales de mi partido

hay esta sensación de que no hay y les he dado antes pruebas en las zonas rurales de álava

más allá de la discusión sobre la comisaría de laguardia pero antes había una comisaría volante que hoy no existe que atendía la zona de valdegovía y había una comisaría

la presencia de la ertzantza en la zona rural alavesa ha decrecido y

que se pongan las medidas ya de facto sino queremos que lo estudien y eso es lo que les estamos diciendo yo aquí a veces el debate

que habíamos dicho alguna barbaridad diciendo que en cada pueblo y detrás de cada ciudadano y ciudadana de la zona rural alavesa había que poner un ertzaina que no señores que estamos en medidas concretas

medidas precisas medidas que creo que responderán a los objetivos que
antes he definido en mi primera intervención muchas gracias eskerrik asko

señor barrio yo no me enfado a mí lo que me ha dado la sensación es que se enfadaba usted porque creía que yo

intente frivolizar mi intervención porque creo que ha sido una intervención seria dice usted que jamás ha hablado de oleada de robos

firmada por don carmelo barrio baroja que creo que es usted y se lo he coloreado por si lo quiere ver oleada de robos

sabe usted cuando hablamos de dotaciones y de patrullas porque se lo hemos explicado la consejera y yo mismos hoy que en la comisaría de laguardia

como mínimo cuatro patrullar veinticuatro horas al día y hasta seis patrullas en momentos de máxima actividad

etcétera y esto se lo digo a usted y se lo digo también al señor

por qué seis patrullas y no siete o cinco o cuatro que son las que hay ahora con qué rigor hacen ustedes esa afirmación porque como el propio señor unzalu ha desvelado su enmienda plantea seis

esa enmienda transaccional se quedaban en cinco entonces con qué rigor estamos abordando este tema de dotaciones

creo además que con esta enmienda que han suscrito generan un agravio comparativo con otras zonas de araba que también tienen amplísimas zonas rurales como puede ser la propia cuadrilla de vitoria o la propia cuadrilla de ayala por no hablar del agravio comparativo

del país alcaldes no quieren se lo digo también porque ustedes hablan de no solamente de alcaldes de concejales

alcaldes que no quieren más presencia policial

en rioja alavesa esa especie de sensación no diré de zona de guerra pero casi y eso incluso no no se rían

incluso el alcalde suyo de labastida ese dice que no quiere no sé por qué razones lo dirá pero dice que ese no quiere más presencia policial en ningún caso lo ha dicho públicamente

le veo le veo hoy hoy hoy muy preocupado por la seguridad de rioja alavesa y de nuestras zonas rurales y por la que según usted plantea la necesidad de más dotaciones en la cuadrilla hombre y digo yo si en el año

cuando ustedes gobernaban el número de delitos en rioja alavesa era muy superior en un tres coma veinticinco por ciento superior a los que ha habido en este año dos mil trece que gobernamos nosotros

medidas que ahora están demandando al departamento de seguridad por qué no lo hicieron señor unzalu sería porque no lo creo pero sería porque no les importaba

de lo que ocurría en ese tiempo del partido socialista en rioja alavesa tampoco lo creo o sería porque a ustedes el sindicato erne claro

cuando gobernaban yo me gustaría que me lo explicara me gustaría que me lo explicara mire en vacaciones conozco personalmente al nagusi de la comisaría de laguardia y le puedo garantizar que esas vacantes que se producen ustedes en julio por vacaciones las cubre con absoluta suficiencia y luego claro habla usted

la aplicación de medidas concretas y las medidas concretas son seis patrullas

digo yo que será el departamento de seguridad con la consejera a la cabeza la que estudie la organización la distribución

y que no sea precisamente usted quien venga a decirle o incluso un sindicato que sea el que venga a decirle cómo tiene que organizar el departamento eso por lo menos

denoi señorías quiero aprovechar esta oportunidad para declarar

que la gran mayoría de este parlamento se opone a los recortes sanitarios que restringen los derechos a la salud

situación administrativa o situación económica la gran mayoría de este parlamento rechaza que alguien pueda quedarse sin tratamiento farmacológico

la gran mayoría de este parlamento denuncia la exclusión de mujeres a tratamientos de fertilidad por criterios establecidos de forma arbitraria por algún gobierno la gran mayoría de este parlamento está en contra de que el derecho a la salud derivado de la libre elección de la maternidad se vulnere

la gran mayoría de este parlamento se opone a que se excluya de la asistencia sanitaria a quienes no cumplen determinados requisitos administrativos

y sean procedentes de otros lugares y hoy la gran mayoría de este parlamento se va a oponer a la última tropelía

y dónde pueden ante la falta de trabajo aquí una pretensión profundamente injusta una vez más como las anteriores y tan injusta como inútil también como las anteriores porque tampoco con esta última medida se va a reducir el gasto sanitario pero es más

en las ocasiones anteriores defendemos de forma radical un servicio sanitario justo equitativo

para quienes residen aquí y para quienes se ven forzados a buscar alternativas fuera de aquí y lo hacemos desde la convicción de que el sistema sanitario público es sostenible lo que lo hace sostenible es la gestión eficaz la adopción de estrategias a medio y largo plazo no la exclusión de personas porque en la exclusión además de la injusticia que rompe los principios del sistema

tiene una derivada aún más costosa en el propio sistema la exclusión hace que el sistema deje de estar vigilante sobre la salud de la población y que enfermedades curables con un simple tratamiento en el domicilio

a través de urgencias la exclusión hace que se generen enfermedades que son evitables mediante la prevención por tanto

el gasto en sanidad y vamos a aplicarlo al tema de la farmacia uno de los copagos que primeramente se ha puesto en marcha como décimos lo que racionaliza el gasto en sanidad

conjuntas de medicamentos o las llamadas subastas de medicamentos como ya se ha demostrado lo que racionaliza el gasto en sanidad es el aumento de recetas en genéricos o la prescripción por principio activo lo que racionaliza el gasto en sanidad es que las medicinas que se expenden en dosis

es la receta electrónica porque permite conocer la adherencia real a los tratamientos y permite un control de la enfermedad de los pacientes crónicos y además ahorra papel lo que racionaliza el gasto en sanidad

para mejorar la evolución y el tratamiento del paciente en el domicilio lo que racionaliza el gasto en sanidad es la prevención la coordinación con las políticas sociales

lo que racionaliza el gasto en sanidad es la reordenación progresiva del sistema

que ya iniciamos en euskadi la pasada legislatura y que se continúa en la actualidad estas políticas por cierto todas ellas fueron apoyadas en este parlamento también por el pp y son las que van a permitir la garantía

universal y de calidad no son las privatizaciones de servicios ni los copagos ni las exclusiones del sistema quienes permiten ahorros

hasta que se nos escuche porque además de la denuncia desde ese primer decretazo hemos estado haciendo uso de toda nuestra capacidad política ilegal

para que esas medidas no se apliquen en euskadi los socialistas lo hicimos tomando decisiones cuando gobernábamos y lo seguimos haciendo ahora desde la oposición impulsando y apoyando determinadas decisiones que van a defender

el servicio sanitario para todos y para quienes no escuchan los datos son indicativos de que estas decisiones son las acertadas

también las sufrimos aquí pero a pesar de ello hemos conseguido no excluir a nadie de la atención universal y de calidad como repetíamos durante la pasada legislatura con menos hemos hecho más

el hecho de que vivamos más años el envejecimiento en definitiva de nuestra población aumenta coherentemente el número de pacientes asistidos y de

bastante mayor que la disponibilidad presupuestaria si hemos sido capaces de atender más y mejor con recursos menguados el gobierno de españa

y si no lo hace es porque tiene un proyecto político para acabar con la sanidad universal pública y de calidad como el pp ha apoyado las políticas sanitarias estratégicas quisiéramos que se sumara la filosofía que las inspira y que las expusiera a su partido en el conjunto de españa

por otro lado nuestro grupo como no podía ser de otra manera discrepa en diferentes proyectos y de la gestión que pueda estar haciendo el actual consejero de salud

la manifestamos de continuo en este parlamento y así lo seguiremos haciendo pero reconocemos que a pesar de sus titubeos iniciales asume esta misma filosofía para impedir exclusiones del sistema ningún problema por tanto para reconocer también en esta ocasión ante el anuncio de retirar la tarjeta a quienes están en desempleo y se ausenten más de tres meses de españa

para decir que euskadi seguiría manteniendo la asistencia a estas personas pero ahora queremos que este modelo sea atendido también en el resto de españa por eso además de rechazar esta nueva exclusión pedimos la retirada de todas las disposiciones legales que limitan el acceso a la asistencia sanitaria a las personas

y que se les garantice la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria del sistema nacional de salud seguimos defendiendo las competencias propias en esta materia con el mantenimiento de la tarjeta sanitaria para quienes

y no reciben prestación por desempleo finalmente

a los grupos eh bildu y pnv con quienes hemos pactado una enmienda de transacción que recoge los valores sociales y sanitarios comunes que entre todos defendemos

y ciudadanas vascas a las que tenemos que dar respuesta personas que además de encontrarse en una situación de desempleo ahora también perderían el derecho a recibir asistencia sanitaria por permanecer en el extranjero más de noventa días en esta situación noventa días que además no tienen por que ser consecutivos

en busca de un futuro bien sea para intentar encontrar una salida laboral o para continuar con su formación académica porque esta disposición también afectará a las y los estudiantes que no cursen estudios reglados y este colectivo se verá seriamente afectado por esta nueva medida del gobierno del españa

en facilitarles formación y su inclusión laboral para que la salida al extranjero sea una opción y no una obligación en definitiva estamos

otra vez atentando contra el derecho a la asistencia sanitaria y ante esta situación el gobierno vasco tiene que tomar una decisión rápida y efectiva para garantizar el mantenimiento de la tarjeta sanitaria a las y los ciudadanos de araba

un ataque frontal al que últimamente nos estamos acostumbrando un ataque que vuelve a vulnerar nuestros derechos y que esta vez afecta directamente al aseguramiento

sí gracias presidenta otra vez hablamos en este parlamento de los recortes del partido popular y otra vez discutimos dos iniciativas que tratan de criticar al menos

nuevas medidas relacionadas con nuevos recortes del partido popular y en este caso concreto dos iniciativas del partido socialista de euskadi y de eh bildu

del sistema sanitario a los ciudadanos que residen temporalmente

exclusión del sistema sanitario a los ciudadanos españoles que residen temporalmente en el exterior porque veo que se señala ciudadanos pero no se dice que efectivamente nos estamos refiriendo a ciudadanos españoles

la justificación de la iniciativa planteada con los argumentos expuestos más allá de la propuesta definitiva y más allá también de la transaccional

compartiríamos alguno de los puntos firmados en esa transaccional pero no todos en concreto estaríamos dispuestos a votar a favor del primero de los puntos

la justificación de la iniciativa del grupo socialista que la crisis económica ha conllevado que sean muchos los ciudadanos que abandonan el país ciudadanos españoles

en busca de las oportunidades laborales y vitales que no encuentran dentro de nuestras fronteras

la crisis económica pero también los recortes sociales impulsados por los diferentes gobiernos y su incapacidad y su negativa a dar la vuelta a la situación de crisis y paro y otorgar esperanza a los ciudadanos especialmente

se dice acertadamente que entre la ciudadanía que ha emigrado forzada por la situación económica y las nefastas consecuencias de la reforma laboral se hayan miles de jóvenes efectivamente la reforma laboral que algunos lumbreras proponen ahora endurecer una reforma fracasada y cruel

que la precarización de las condiciones laborales empleos precarios y temporalidad cualquier cosa menos lo que dijeron que provocaría ni empleo estable

lo contrario se dice también que aunque ha sido reiterada la solicitud al gobierno de españa para que trace un plan de medidas que por una parte ayude a quienes han salido del país en su estancia en el exterior y que por otra parte genere

el gobierno de españa no ha incluido ni una sola política pública en ninguno de estos dos sentidos y efectivamente así es ni ayuda a los que han salido ni incentivos para su retorno pero tampoco lucha

contra la exclusión ni lucha contra la pobreza más bien justo lo contrario pasividad y más crueldad y ahora tal como se dice en la justificación el gobierno de rajoy

que contempla la perdida de residencia a efectos de prestaciones de la seguridad social incluidos los complementos a mínimos a quienes superen los noventa días de estancia en el extranjero en un año natural y así la modificación introducida establece que a efectos de mantenimiento

se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en españa aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los noventa días de cada año natural en fin etcétera etcétera todo lo que se plantee en esta justificación que está perfectamente explicado y que nosotros

conllevan la exclusión de la condición de residentes en españa de quienes pasen más de noventa días fuera de nuestras fronteras que efectivamente no hace falta que sean consecutivos como aquí

del derecho a acceder al sistema sanitario una nueva exclusión con el agravante de dirigirse precisamente a un colectivo el joven que por su especial situación

precisa de un mayor apoyo de los poderes públicos y se termina señalando acertadamente que este parlamento se ha manifestado de forma mayoritaria y contundente

y hoy también volverá a hacerlo a partir de ahí la propuesta del grupo socialista y también nuestra propia enmienda que va en la misma línea de oponernos a este nuevo recorte social impulsado por el partido popular la enmienda

no se aplique esta disposición a la ciudadanía de la capv en nuestra opinión no se trata de que no se aplique esta disposición

que también si se quiere sobre todo lo que se pretende o se debería pretender a nadie a ningún ciudadano y la mejor vía para echar atrás esta iniciativa en nuestra opinión es tratar de defender esta misma iniciativa

muy parecida a esta ya registrada en el congreso de los diputados desde hace mes y medio y que se discutirá en los próximos días en relación a la enmienda del grupo nacionalista vasco se señala habitualmente suele señalarse cuando debatimos estos asuntos que el gobierno español no respeta nuestro autogobierno y vulnera las competencias en materia sanitaria

lo fundamental son las políticas de recortes lo fundamental es que el gobierno de españa vulnera derechos e impulsa recortes y esto es lo que debemos hacer tratar de impedir no se trata de fraccionar el país en diferentes ciudadanías

algunos ciudadanos mantengan determinados derechos y otros no se trata de mantener los derechos de todos los ciudadanos del mismo país del que somos ciudadanos es decir españa ese es el objetivo fundamental por lo tanto no es buen camino tratar de fraccionar y tratar de ahondar en las desigualdades aunque entiendo

al menos lo que ocurre en determinada región pero el camino tiene que ser más amplio el camino debe ser tratar de defender los derechos de ciudadanía en el conjunto del país y el objetivo pues señor

no es seguir trabajando para garantizar un sistema vasco de salud público y de calidad

el objetivo es garantizar un sistema de sanidad público y de calidad sin excepciones en el conjunto del país sabemos que es complicado porque el partido popular tiene una mayoría absoluta evidentemente pero podemos hacer también desde aquí creo que pedagogía y tratar de defender los derechos de los ciudadanos del conjunto del país ya decía antes que nosotros tenemos una iniciativa registrada en el congreso desde el pasado día trece de enero de dos mil catorce que va en esa línea de posicionarnos en contra de este nuevo recorte donde damos una serie de datos que son relevantes en relación a qué tipo de personas

en los últimos tiempos y donde señalamos que es más necesaria que nunca

incluyendo en ese sentido la asistencia sanitaria a los españoles que viven en el exterior es decir en ese sentido pues lógicamente estamos de acuerdo con la mayoría de este

a la justificación de la iniciativa del grupo socialista y a los argumentos que se han

más allá quizás de añadir que se trata de una nueva muestra de la deshumanización de las políticas del gobierno de españa al dejar desprotegidas a personas que se ven forzadas

o se van por distintas razones básicamente por la situación de precariedad en la que se encuentra el país se van y por eso se trata de defender también sus derechos y dicho esto yo planteo aquí básicamente dos dudas para terminar por un lado el ahorro que provocaría esta medida desconocemos el ahorro

desconoce el supuesto ahorro que esta medida plantearía que además de ser una medida es un recorte evidente pero tampoco tenemos ese dato y

quién y cómo va a controlar que las personas pasan más de noventa días fuera de españa desde la seguridad social señalan que la administración tiene sus procedimientos y los aplicará pero sin más concreciones es decir en principio no hay ningún mecanismo específico para llevar a cabo ese control españa tiene conocimiento de que uno de sus ciudadanos está en el extranjero si por ejemplo se inscribe en algún consulado sino

desconocemos el ahorro desconocemos la justificación desconocemos para qué este nuevo recorte para qué qué nos

que tampoco estaríamos de acuerdo sea cuanto sea ese recorte y tampoco

controlaría este asunto cómo estaría dispuesto a controlar este asunto el gobierno de españa por lo tanto una medida

injusta poco eficaz poco eficiente y claramente innecesaria y para terminar y añadiendo también que en todo caso

y una nueva medida a la que nosotros nos oponemos contundentemente

que con menos hacemos más y no es así esto no es así en ninguno de los sentidos eso de que con menos hacemos más aquí también ha habido recortes aquí también ha habido recortes y aunque tenemos menos recursos que antes

menos recursos que el resto de los ciudadanos españoles sino más y es una de las razones por la cual podemos cubrir determinadas prestaciones que recortan fuera
eso también hay que decirlo nosotros podemos defender determinadas prestaciones amaitzen joan maneiro jauna porque tenemos más recursos que el resto de los ciudadanos españoles

habría campo donde avanzar en todo caso ya digo oposición contundente

tienen garantizada la asistencia sanitaria en nuestro país porque así lo ha establecido por primera vez un gobierno el gobierno del partido popular y de acuerdo a los reglamentos europeos la enmienda introducida a los presupuestos no afecta

esta medida precisamente quiere acabar con la mala aplicación de la normativa europea que hacía que ciudadanos extranjeros que agotaban sus prestaciones o estaban en paro y que se iban a otros países o al suyo de origen siguieran utilizando la tarjeta española sin límite de tiempo

se ha hecho algo lógico limitar el derecho a la tarjeta sanitaria a aquellos ciudadanos que ya no eran residentes en españa y que antes con el gobierno del partido socialista cuando se iban tenían derecho a solicitar que se les cubriera la asistencia sanitaria sin límite de tiempo y con cargo a nuestro sistema estas estaban recibiendo en otro país fuera de nuestro país de españa asistencia sanitaria pero girando las facturas a españa

esa asistencia sanitaria por ello el gobierno socialista

y no traspuso la directiva comunitaria correspondiente que nos llevó

situación ya lo puso de manifiesto el pleno del tribunal de cuentas en un prolijo informe en donde ya constató las consecuencias de esta negligencia de no haber traspuesto debidamente como decía esta directiva comunitaria

mil millónes de euros cada año por atender

que se habían marchado a sus países de origen ahí tiene usted señor maneiro el dato del ahorro

según el informe del tribunal vasco de cuentas lo tengo ahí luego se lo muestro no tengo ningún inconveniente por atender

extranjeros que se habían marchado a sus países de origen además por incorporar algunos otros datos al debate irregularidades que este gobierno ha tenido que subsanar el cruce cuarenta y cinco millónes de tarjetas llevada a cabo por el gobierno ha descubierto que había

que eran beneficiarios de otras personas y estaban en activo de ellos

de un pensionista con un coste aproximado de veintiocho millónes de euros anuales señor maneiro aquí tiene otro dato del ahorro

además había quinientos cincuenta y dos mil tarjetas emitidas para personas sin recursos

sí los tenían estas son las irregularidades constatadas por el gobierno del partido popular y precisamente el decreto dieciséis barra dos mil doce

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones ha establecido medidas concretas para garantizar la sostenibilidad a la que usted hacía referencia señora roncal

millónes de euros con la que dejaron ustedes que se dice pronto

y empezar a poner solución a esta serie de irregularidades que acabo de constatar en definitiva un sistema mucho más justo equitativo y solidario

han recogido las recomendaciones del tribunal de cuentas y se han aplicado las disposiciones europeas que ustedes señores socialistas no aplicaron

se ha incorporado la directiva dos mil cuatro barra treinta y ocho

aprobada durante su gobierno y desatendida por ustedes esta directiva habilita a los estados miembros

a los ciudadanos comunitarios no nacionales para permanecer en su territorio por un periodo superior a noventa días también se han aplicado los reglamentos europeos en la seguridad social aprobados en dos mil cuatro y dos mil nueve y negociados por el partido socialista

que son los que marcan las reglas para la asistencia sanitaria en desplazamientos y autorización de residencia

el sistema es verdaderamente universal y los españoles con independencia de su lugar de residencia tienen acceso a una cobertura gratuita

profesionales como arquitectos abogados ingenieros tienen derecho a la asistencia sanitaria cuando antes estaban excluidos esa es la realidad señorías los desempleados de larga duración que han agotado sus prestaciones tienen derecho a la tarjeta sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los españoles

no tienen que pagar sus medicamentos como lo hacían con el gobierno del partido socialista donde pagaban el cuarenta por ciento de sus medicinas por lo tanto ahora hay un sistema mucho más justo

solidario con aquellos que menos recursos tienen y peor lo están pasando ahora tienen cobertura sanitaria los ciudadanos extranjeros residentes en españa antes tenían cobertura sanitaria por el mero hecho de empadronarse

sin ningún otro requisito lo que ocasionaba que como la tarjeta sanitaria confiere derechos a futuro

se fueran a sus países de origen y los gastos en la asistencia sanitaria en sus países de origen se revertían se pasaba la factura a la sanidad sistema nacional de salud

situación irregular creo que ha salido a colación o sino me imagino que saldrá luego tienen una de las asistencias sanitarias

países de la unión europea donde los extranjeros en situación irregular tengan una mejor atención sanitaria que en españa se ha aclarado

para que se hagan cargo los países de los gastos sanitarios de los extranjeros que se van de nuestro país es que antes no había límite y por tanto vienen esos mil millónes de euros a los que antes hacía referencia constatados en un informe del tribunal de cuentas de los que nos hacíamos cargo los españoles

de nuestro país la cobertura sanitaria señorías lo que se ha intentado es acabar con el mal uso de la tarjeta sanitaria y por aclarar los ciudadanos españoles que se desplazan temporalmente a países de la unión europea espacio económico europeo y suiza

viajes o intercambios tienen asistencia sanitaria garantizada a través de la tarjeta sanitaria europea o del certificado provisional sustitutorio esa es la realidad señorías los que tienen empleo en otro país tienen su sanidad cubierta por los sistemas de salud del lugar

cuando vienen a españa por ejemplo a pasar sus vacaciones tienen garantizada la asistencia sanitaria a través de la tarjeta sanitaria europea por los países en los que trabajan vuelvan a residir aquí tienen de nuevo su tarjeta sanitaria en españa los estudiantes que se desplazan a otros países europeos

tienen la asistencia sanitaria cubierta por la asistencia sanitaria o los seguros

y en cuanto a las personas en paro que se desplazan a otros países primero en españa siempre tienen asistencia sanitaria igual que el resto de los españoles

un máximo de noventa días al año a través del certificado provisional sustitutorio y si están más de esos tres meses de esos noventa días

la legislación aplicable es la del país de residencia de acuerdo con reglamentos comunitarios aprobados cuando el partido socialista gobernaba por lo tanto esa es la realidad y si estas personas volvieran a españa en el momento de su vuelta recuperarían la condición de asegurado por lo tanto señorías esta es la mera realidad que se desprende de toda la normativa aprobado a raíz también del decreto de sostenibilidad se ha intentado garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud

de fraude y los abusos y ha posibilitado un ahorro y que realmente el dinero

por gastos que no nos tenemos que hacer cargo los españoles y que ese dinero

como por ejemplo poder incrementar las pensiones esas que el partido socialista congeló por ejemplo a financiar medicamentos innovadores no sé de qué se sorprende usted señora roncal que debe de estar al día sabrá esta cuestión muchas otras cuestiones por lo tanto señorías nada de demagogia ni alarma social porque esta es la realidad
y estas son las medidas amaitzen joan garrido andrea nada más y muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

sí en primer lugar dar las gracias a todos aquellos que se han posicionado a favor de defender

para los ciudadanos me refiero al grupo parlamentario del partido popular al grupo parlamentario de eh bildu

socialista que vamos a apoyar esta transacción aprobada entre los tres

maneiro también agradecerle su posición y

posicionamiento más importante de rechazo a todos los recortes señora garrido produce rubor venir aquí y escuchar las barbaridades que ha dicho usted pura demagogia como usted pretende decir

determinados campos de mejora o en el que hubiera que corregir determinados abusos pero oiga ustedes han matado moscas a cañonazos y tener aquí la cara de decir que con los ahorros van a mejorar las pensiones

en el año dos mil catorce ha subido más el porcentaje que hay que abonar de copago que el porcentaje de la pensión

dígame usted dónde está esa repercusión a favor de los pensionistas que pretende usted con esos ahorros

insisto todas las decisiones que ha tomado el partido popular han ido exclusivamente a restringir los derechos de los ciudadanos de ninguna manera

más sostenible el sistema y quiero decirle otra cosa cada vez que usted alega a la deuda sanitaria

quienes son gestores de la sanidad que no es el gobierno de españa

entre ellas algunas por cierto con deuda bastante importante

por tanto sea usted más humilde y cuando hable de la deuda acumulada

que en ella han participado buen número de comunidades autónomas sencillamente

y lo que me enorgullezco es de que este parlamento en su gran mayoría defienda

sobre toda la protección de la salud y que los servicios que se ofrecen desde los poderes públicos no restrinjan no recorten derechos y mantengan

para compensar la situación catastrófica generada por la falta de empleo que no sean las políticas públicas de sanidad

educación y pensiones quienes agraven más la situación de vulnerabilidad en la que está este grupo de población nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

berriro señora garrido cada vez que hablamos de estos temas tiene usted la capacidad de darle la vuelta de tal manera

los españoles y españolas tienen garantizada la asistencia sanitaria los vascos y las vascas también siempre y cuando

y tengamos que salir al extranjero por una cuestión o por otra y estemos más de noventa días desempleadas entonces nos quedaremos sin asistencia sanitaria qué se puede volver a solicitar

lleva su tiempo y las personas que tiene que volver a tramitarlas se verán envueltas seguramente en una maraña burocrática gracias a la cual quedarán en un limbo administrativo

nosotros lo hemos hablado y le vuelvo a repetir de las personas de los jóvenes de las personas que sales de nuestro territorio para buscar activamente empleo

económico del que disponían para poder buscarse la vida los estudiantes sí los que cursan erasmus sí también se lo he dicho en mi primera intervención es que parece que no me ha escuchado

ni demagogia ni alarma social realidad mire estamos

ustedes apuestan por el recorte de derechos amparándose en el ahorro y enfrente

denunciando la vulneración de derechos tan básicos como el derecho a la salud eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias vamos a ver si entre todos conseguimos reconducir

no disperse los asuntos para disimular como habitualmente hace vamos a ver la iniciativa que upyd ha presentado en el congreso de los diputados escúchela y dígame por favor si usted estaría de acuerdo con ella garantizar el acceso a la sanidad a los ciudadanos de nacionalidad española residentes en el extranjero que carezcan de dicha cobertura por cualquier motivo en los países de destino de forma semejante

en territorio español está usted de acuerdo con esto o no no es que de esto estamos hablando no de lo que ha hecho el partido socialista o no garantizar el acceso a la sanidad de los ciudadanos de nacionalidad española residentes en el extranjero y que carezcan de cobertura sanitaria por cualquier motivo en los países de destino de forma semejante a si tuviesen su residencia en territorio español la enmienda planteada upyd el problema es que en algunas iniciativas como se evita poner español por cualquier lado claro a veces lleva a la equivocación pero estamos hablando de lo que estamos hablando y de lo que ha provocado esta modificación legal del gobierno del pp no estamos hablando de las equivocaciones

de esta cuestión no hablamos de residentes extranjeros que se marchan fuera sino de ciudadanos españoles que marchan fuera

evidentemente señala los errores del partido socialista que ha habido y muchos pero no asume los suyos por lo tanto no mezcle temas no confunda no hablamos de residentes extranjeros aprovechateguis que se van fuera estamos hablando de ciudadanos españoles que se van fuera

quien no tenga un contrato legal en su nuevo país de residencia o esté cursando un estudio homologado tendrá que costearse su propio tratamiento está usted de acuerdo con esto

partido popular a nosotros no hasta ahora si una persona tenía la residencia española y la tarjeta sanitaria y se marchaba al extranjero españa se hacía cargo de su atención médica

en tu nuevo país de residencia españa no se hará cargo de esto estamos hablando y evidentemente esto afecta especialmente a las personas que se marchan fuera de españa

no tengan un contrato de trabajo es muy probable que esas personas no generen el derecho a la sanidad allí donde residan y al mismo tiempo pierdan su tarjeta española y nosotros no queremos que pierdan esa tarjeta española señora garrido personas que estén de un puesto de trabajo o que cursen algún estudio no reglado también se verán afectadas se verán afectadas o no se verán afectadas señora garrido sí se verán afectadas de esto estamos hablando cuando esas personas

la podrán recuperar si cumplen unas determinadas condiciones

que cumplen con alguno de los requisitos para ser asegurado el proceso para solicitar nuevamente esa tarjeta es un auténtico calvario

calvario y por lo tanto esta es la justificación de la iniciativa esto es lo que nosotros queremos apoyar con nuestro voto al votar el primero de los puntos de la transaccional

este es un asunto lo suficientemente importante como para no plantearlo de

es decir que la comunidad autónoma que pueda

que cada una de las comunidades autónomas trate de salvaguardar los derechos

esto no se soluciona así se soluciona con una visión de conjunto y por eso no estamos de acuerdo con medidas que pretenden fraccionar la ciudadanía

traten de asegurar la cobertura sanitaria de los ciudadanos que vivan en esa comunidad

del conjunto del país no hay que fragmentar por lo tanto la

algo que tanto les gusta a los nacionalistas y en demasiadas ocasiones al partido socialista en sus diferentes versiones regionales y en función de dónde gobiernan al portavoz del partido nacionalista vasco le hemos escuchado hablar más de autogobierno

y cuestiones semejantes que de garantizar los derechos de los ciudadanos y una sanidad universal y de calidad esto es lo importante esto es lo fundamental de esto es de lo que creo que ustedes deberían hablar más en todo caso para nosotros es lo fundamental y por eso vamos a votar

eskerrik asko presidente andrea en resumen lo que nosotros no queremos es que

se degrade a través de medidas que no han sido ni negociadas ni consensuadas con nuestros representantes institucionales

señora garrido señor maneiro no estamos en el congreso de los diputados estamos en el parlamento vasco lo cierto es que el gobierno de españa tanto el actual como el anterior e incluso en un hipotético caso si fuera el de upyd

se ha visto obligado a adoptar medidas que han llamado reformas pero que realmente no son más que medidas de cara a cuadrar sus cuentas para cumplir los requisitos establecidos por la unión europea

se les ha exigido para poder financiar la deuda contraída y en consecuencia están obligados a seguir las pautas que les está marcando

de compensación por esas ayudas en abril del año dos mil doce cuando se aprobó el real decreto

el gobierno del partido popular argumentaba que se podrían conseguir unos ahorros

pero son cifras que no se sustentan en ningún dato concreto no aparece

o de dónde se va a sacar esas cantidades de hecho el real decreto ley

pero lo cierto es que la deuda sanitaria acumulada en algunas comunidades autónomas

por aquellas fechas a quince mil setecientos millónes además con un retraso

entorno a los cuatrocientos días en contraposición a esa situación en euskadi la situación era totalmente diferente el panorama ha sido totalmente diferente pero da igual se decidió aplicar tabla rasa

las medidas las mismas para todas las comunidades por igual

nosotros no entendemos que sea dar a todos lo mismo sino que dar a cada uno lo suyo lo que le corresponde entendemos que estas medidas que se pretenden imponer por igual a todas las comunidades autónomas se han adoptado sin consenso

no ha habido ningún debate en el parlamento español en el congreso español

sino por la vía del real decreto ley llegamos a la conclusión o parece que da la sensación de que se ha aprovechado esta circunstancia para aplicar un giro ideológico en la concepción del estado y proceder a su recentralización

por lo tanto entendemos también que se está intentando pasar de un sistema sanitario con vocación de carácter universal a uno vinculado

que es lo que precisamente nosotros no compartimos se está acortando el camino avanzado

lo que supone un atraso en cuanto a los logros en lo referente a los derechos sociales no lo décimos solo nosotros ya se lo he dicho anteriormente comité europeo de los derechos sociales se lo ha recordado recientemente el mes pasado más concretamente por lo tanto señora garrido

debatiendo hoy en esta cámara no son para mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario sino que son medidas para hacer frente a una serie de necesidades económicas desde luego no aportan nada al sistema vasco público de salud y yo creo que es el momento

de posición y realmente explique a sus votantes a ver qué es lo que aportan esas medidas

al igual que en otras comunidades autónomas que parten de una situación totalmente diferente por lo tanto sin más

de diferencias ideológicas sino de arreglar la desastrosa situación que encontró el gobierno del partido popular

de euros de déficit y hacia usted referencia a los proveedores sí efectivamente independientemente ya de porque hacía referencia la señora roncal al tema de las comunidades debido incapacidad del partido socialista ha sido el gobierno del partido popular el que ha tenido que arbitrar planes específicos de pago a proveedores para salvar a comunidades autónomas

autónomos muchos pequeños negocios no se hundieran porque tenían deudas y también de la sanidad y podemos sin más ni menos a los datos de andalucía y cómo estaban las cifras y cómo estaba el pago a proveedores y sí

del partido socialista y sobre todo la negligencia de no haber transpuesto debidamente la normativa comunitaria

una vez que se iban a su país de origen se pasaba la factura a españa eso no pasa en ningún país de la unión europea eso según el tribunal vasco de cuentas

ciudadanos todos los años he aportado también el dato de que el cruce de cuarenta y cinco millónes de tarjetas llevado

esto todo pues el partido socialista hacía oídos sordos y respecto

sin más ha sido siguiendo las recomendaciones del tribunal de cuentas viendo esos datos

por estar haciéndonos cargo de gastos que no nos correspondían y sobre todo por dar cumplimiento a aquellas directivas comunitarias y a aquellos reglamentos comunitarios que ustedes negociaron señora roncal si fueron los que ustedes

y claro cuando el partido socialista me habla de que es un sistema menos justo menos equitativo menos solidario yo creo que para muestra un botón con ustedes

con ustedes los desempleados no tenían garantizada la cobertura sanitaria igual que el resto de los españoles ha sido un gobierno del partido popular el que ha posibilitado que los parados sin prestación que antes con ustedes pagaban el cuarenta por ciento

ha sido con un gobierno del partido popular el que ha hecho posible que los parados sin prestación que antes no tenían garantizada la asistencia sanitaria igual que el resto de los españoles ahora la tengan posible que profesionales como médicos arquitectos ingenieros que antes no tenían garantizada la asistencia sanitaria ahora la tengan y esa es la realidad señora roncal y esa es la realidad y los datos del ahorro señor maneiro a los que usted me hacía referencia ahí están

y ese dinero se ha podido destinar a financiar medicamentos

precisamente lo que no hacía el partido socialista y para finalizar

dar lectura a algo a lo que ya he hecho referencia en otras ocasiones

los extranjeros que necesitan visado para entrar en la unión europea deben traer un visado en vigor donde figura el tiempo de duración de la estancia

los extranjeros que no necesitan visado tienen que acreditar que llevan noventa días en la unión europea

por tanto evidentemente tienen que ser regulares ningún extranjero en situación de estancia aún estando empadronado se puede acoger a la asistencia sanitaria al amparo del decreto

si tenéis alguna duda poneros en contacto con el departamento de tarjeta sanitaria

a propósito de esta cuestión y es lo que decía el señor bengoa en una respuesta parlamentaria y la circular que remitió a todos los centros de salud del país vasco cuando ustedes